y en cambio constante los avances en la materia de la información y la comunicación revolucionan nuestras vidas nadie ni ciudadanía

quiere ni puede quedarse atrás nos consta que las administraciones públicas y en concreto la administración vasca avanzan ya en este camino hacia la

ágil eficaz y moderna dirigida a prestar unos mejores servicios públicos a la ciudadanía y en este camino es donde se enmarca el plan estratégico de gobernanza innovación pública

y dentro de este plan estratégico entendemos que el plan global de

resulta esencial para avanzar en este camino y sobre ello señor consejero le queremos preguntar hoy sobre su ejecución y resultados horrela sailburu jauna

un nuevo modelo de gestión de las tic en el ámbito del sector público autonómico un modelo que va a contribuir a mejorar notablemente la prestación de servicios que nos va a permitir retener el control y la información estratégica en manos del propio sector público

importante el proyecto es fruto del trabajo desarrollado durante los últimos años últimos cinco años pero sobre la base de la experiencia acumulada

una experiencia que ha evidenciado la necesidad de contar con una planificación estratégica común y coordinada por parte de las entidades que conforman el sector público de la comunidad autónoma de euskadi una planificación que permita efectivamente la interoperabilidad y la interdependencia real entre las administraciones públicas

se proyecta en cuatro ámbitos diferentes uno infraestructuras dos comunicaciones tres puestos de trabajo y cuatro servicios corporativos unificados por lo que respeta a las infraestructuras en apenas dos años

que no en un único cpd ello nos va a permitir contar con una estructura cpd moderna con tecnología

también hemos incorporado el paradigma cloud o nube a la gestión de las infraestructuras lo que nos ha permitido

el gasto en las infraestructuras físicas y finalmente se ha unificado también la contratación de los servicios de soporte lo que nos permite prestar el modelo el mejor modelo de servicio

y con una misma persona dando servicio a las diferentes entidades en lo concerniente a las comunicaciones estamos poniendo a disposición de todas las entidades un catálogo común de seguridad y de comunicaciones

a nuevos escenarios de movilidad mediante la virtualización de cada uno de ellos

a los servicios corporativos unificados hemos puesto en funcionamiento soluciones comunes de correo y de colaboración

un proyecto de decreto que permita dar cobertura jurídica a las actuaciones que estamos llevando a cabo

que permitan racionalizar los gastos de la administración pública porque si la actuación administrativa debe guiarse siempre en todo momento

en la actual coyuntura económica es vital optimizar el aprovechamiento y obtener el máximo valor de los recursos públicos eskerrik asko eskerrik asko

honela esaten nion me preocupa que el nacionalismo supremacista y excluyente adquiera protagonismo y se imponga a toda costa

o en el interior de un estado eta jarraitzen nuen el ideal del autogobierno se encuentra en la concordia y convivencia entre identidades diferentes desde el respeto y el reconocimiento mutuo nion

edo itxi batekin la visión supremacista o excluyente no tiene nada que ver con nuestro ideario hemos defendido siempre

hemos recorrido el camino de la democracia el autogobierno y la integración europea también de la mano del partido socialista desde el primer gobierno vasco

luchamos contra lo que representan le pen y salvini

y hemos compartido el gobierno de las instituciones vascas también ahora los hechos avalan esta trayectoria democrática y de defensa de la pluralidad

general del partido socialista de euskadi haya querido cuestionar con sus palabras toda esta trayectoria de hechos las palabras son importantes pero tanto o más son los hechos y pido coherencia ustedes por ejemplo están ensalzando las reuniones de arnaldo otegi con eguiguren o rodríguez zapatero

con la propia idoia mendia lo hicieron para hablar del presupuesto poniendo el foco precisamente en los hechos más que en las palabras eso es lo importante eskerrik asko

señor martínez pues de la misma forma que lo venimos haciendo desde el primer día que a mí me correspondió ser lehendakari desde la legislatura pasada y también en esta legislatura

con la mayor humildad posible con diálogo abierto con todos los grupos con voluntad de acuerdo y sobre todo con mucho trabajo eskerrik asko eskerrik asko

lehendakari ayer mismo su gobierno volvía a perder una votación en esta cámara
y ya van cinco y llevamos tres plenos no hay pleno que salven sin evidenciar que están en minoría en minoría y sobre todo y sin capacidad de diálogo porque esas derrotas parlamentarias y dificultades para sacar a adelante los presupuestos la reforma de la rgi

la ley de transparencia la modificación de policía no es solo que pnv y pse no sumen mayoría es que

a dialogar y a llegar a acuerdos incluso hoy hemos visto cómo le piden que se deshaga de su socio de gobierno

proponiendo a su gobierno que habláramos de presupuestos me comprometí a presentar nuestras propuestas usted lo solicitó también y así lo hizo elkarrekin podemos

que diez días después de haberles entregado la plataforma de negociación

la opinión o hemos recibido una llamada del señor consejero de hacienda el señor azpiazu me centro en el señor azpiazu porque sí que es cierto

ni dos horas en desecharlas inventándose así poniendo el dedo al aire una cifra de mil quinientos millónes de euros que no se sabe de dónde la sacaron

desde su partido que exigimos más aquí que en madrid que por qué no metemos la naval en los presupuestos generales del estado

que si el acuerdo que se ha conseguido en el estado no es agenda vasca a pesar de beneficiar a cuatrocientos mil ciudadanos y ciudadanas de este país solo les ha faltado esta semana culparnos de los hongos de los pinos

incluso con esta soberbia están llegando ustedes al punto al que están llegando hoy su gobierno pierde votaciones ve imposible cumplir con su propio calendario legislativo

y todo esto porque a día de hoy es incapaz de llegar a acuerdos ayer mismo recibieron

que vista las rebajas de otoño de euskal herria bildu les saldrá más barato conseguir dos abstenciones que tener que dar un giro de ciento ochenta grados a sus políticas y obtener con ello el apoyo de elkarrekin podemos

son ustedes los que están poniendo el barco de su gobierno rumbo a la prórroga de presupuestos y serán ustedes solo ustedes los responsables

pero le diré una cosa aquí tiene una mano tendida para reunirnos para dialogar y para ver las posibilidades de acuerdo

que exige ese giro social de su gobierno

como es suya y de nadie más la responsabilidad que haya prórroga o no y si hay acuerdo con quién será

señor martínez ha hecho usted una apelación a lo que dijo en el debate de política general y yo también le voy a hacer la misma apelación a lo que le respondí en el debate de política general yo le dije no dice verdad señor martínez no dice verdad hace usted referencia a la pérdida de una votación ayer y por qué no hace referencia a las ganancias o a las votaciones ganadas

a las votaciones ganadas en todo caso insisto en el espíritu

hemos aprobado los presupuestos entre dos mil catorce y dos mil dieciocho en el tiempo que me ha correspondido ser lehendakari

señor martínez el mismo espíritu nos anima en el proceso de aprobación de los presupuestos del año que viene dos mil diecinueve unos presupuestos expansivos

las políticas sociales y la mejora de la competitividad de nuestra economía unos presupuestos positivos para la ciudadanía y en cuanto al calendario legislativo al que ha hecho referencia también la responsabilidad y compromiso del gobierno es aprobar y presentar

en el consejo de gobierno y nos encontramos en el ecuador de la legislatura hemos aprobado diez proyectos de ley siete en forma de proyecto y tres de proposición de ley

en doce nuevos anteproyectos de ley que serán aprobados en los próximos meses en total suman veinticinco y vamos a aprobar los veintiocho proyectos de ley comprometidos

las hemos analizado y tendremos ocasión también de debatirlas con el grupo parlamentario elkarrekin podemos como con todos los grupos nuestra actitud sigue siendo de mano tendida porque somos conscientes

y también los presupuestos no planteamos líneas rojas ni renuncias excluyentes como ustedes hicieron también en el debate de política general solo pedimos

por sus compañeros y compañeras de otras comunidades señor martínez realismo con el escenario de ingresos fiscales aprobado en el consejo vasco de finanzas y

los recursos públicos en un escenario de consolidación y equilibrio fiscal conforme a las directrices europeas solo pedimos el mismo respeto realismo y responsabilidad

unidos podemos para acordar un proyecto de presupuestos generales y remitirlo a europa para su validación señor martínez nuestra puerta

usted sabe que aprobar los presupuestos en euskadi es tan importante como aprobarlos en españa o en cataluña el acuerdo

consejero nadie duda hoy del peso que la actividad comercial tiene en términos de creación de empleo y de riqueza en el conjunto de las economías modernas en concreto en euskadi el comercio representa a día de hoy el once por ciento del producto interior bruto y el plan estratégico de turismo comercio y consumo establece que en el ámbito del comercio uno de los ejes estratégicos es el impulso de su competitividad el comercio vasco juega un importante papel vertebrador en nuestra economía

sin embargo la percepción social de esta realidad resulta actualmente

un hecho que no favorece la captación del talento transformador en el sector y por eso una de las líneas de actuación presupuestaria para este año del departamento de turismo comercio y consumo está dirigida a potenciar el fomento del emprendimiento y a hacer que euskadi resulte lo suficientemente atractiva no solo para captar inversión sino para el desarrollo de nuestro talento propio usted señor retortillo como consejero se comprometió en los actuales presupuestos favorecer

creando para ello una nueva línea de ayudas tanto para quien inicia una actividad comercial como para quien amplia sus líneas de negocio el talento de los emprendedores es junto con la sucesión empresarial y el acompañamiento una parte fundamental del futuro del sector comercial

y cada vez también más competitivo y por eso el pasado dos de octubre presentaba usted en el consejo de gobierno un nuevo programa de ayudas para el emprendimiento comercial con el objetivo de proporcionar un impulso necesario absolutamente necesario

de autónomos y de empresas y a los socialistas vascos nos parece importante esta iniciativa por dos consideraciones una porque se cumple así con un compromiso presupuestario

y con la sociedad vasca también y segundo porque se responde a una demanda histórica del sector comercial vasco con una apuesta clara por la excelencia empresarial y por la innovación en el comercio de proximidad buscando también

tanto en el aspecto económico como en el ámbito social habiéndose encontrado además una fórmula que favorece que impulsa el emprendizaje femenino y como este programa tiene abierta a día de hoy su convocatoria

lo más completo posible de las características de estas ayudas y de este programa de emprendizaje del comercio vasco que ha puesto en marcha su departamento gracias eskerrik asko corcuera

lehendakari consejero consejeras señorías señora corcuera

a una larga demanda del sector comercial en euskadi referida no ya a los operadores establecidos si no a quienes se quieren incorporar con nuevas ideas de negocio

de comercialización con productos novedosos y con ilusión

tan necesario siempre en cualquier actividad económica y desde luego también en comercio con este programa que efectivamente es nuevo y que demuestra las cosas que hace este gobierno y por lo tanto agradezco su pregunta precisamente para ello

este programa decía queremos favorecer el emprendimiento como una línea que soporte la renovación del parque comercial integrando elementos globales de apoyo específico al impulso de comercios innovadores este programa debe servir para propiciar proyectos comerciales singulares de emprendimiento tanto para nuevos comercios como para permitir

lo que ofrecemos a las personas destinatarias es soporte financiero y también asesoramiento el programa además busca sinergias y colaboración con las áreas

y con iniciativas también de carácter privado este programa permite el diseño singular para cada acción sumando y coordinando tanto a los agentes sectoriales o zonales como a los institucionales como se recoge en las bases las ayudas dan prioridad a actuaciones que o bien se desarrollen en áreas locales en riesgo de exclusión

o que se dirijan a colectivos a los que les sea más difícil iniciar una actividad empresarial o su inserción en el mercado laboral por tanto con estas ayudas también ponemos el foco

más desprotegidas y efectivamente también incide en la incorporación de la mujer aumentando el número de proyectos empresariales promovidos por mujeres al reservar

a proyectos liderados por mujeres el programa cuenta con una dotación total de dos coma dos millónes de euros

hasta el setenta por ciento subvencionable admitido con un total

a cubrir gastos que para muchos puedan constituir una barrera para abordar el emprendizaje comercial registro notaría asesoría etcétera también para cubrir los gastos de puesta en marcha o también para subvencionar asimismo inversiones en obras mobiliario equipamiento así como soluciones tecnológicas otra línea de programa se destina a financiar proyectos de los ayuntamientos vascos que busquen fomentar la viabilidad comercial

en sus municipios para finalizar me parece importante subrayar que en solo una semana el programa ha obtenido una extraordinaria acogida

comercial presentados y hasta una veintena de ayuntamientos ya nos han comunicado también su intención

o favorecer el emprendimiento comercial en sus municipios el plazo

animar a seguir presentando propuestas en esta convocatoria a aquellas personas con proyectos de emprendimiento comercial que puedan contribuir a la revitalización

tan importante es también para la vida en nuestros barrios en nuestros pueblos y en nuestras ciudades eskerrik asko eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta señorías señor lehendakari

y cuyo principal artífice pues fue pablo iglesias y el partido podemos que llegó a un acuerdo nada menos que con el gobierno de españa presupuestos

casi presupuestos diría yo de fantasía prevén incremento en el gasto prevén también un incremento desaforado en los ingresos tributarios porque suben los impuestos precisamente a las clases medias

regresivos que amenazan el crecimiento económico que ya da

no solamente en el conjunto de españa sino también aquí en euskadi me interesa conocer su opinión conozco la del presidente de su partido

y también ha anunciado que su partido va a ser un socio fácil en madrid
y yo le pregunto a usted qué le parece en qué cree que nos benefician esos presupuestos aquí eskerrik asko

legebiltzar buru andrea señor alonso mire todavía no conocemos

la propuesta de presupuestos generales del estado para el próximo año dos mil diecinueve en cualquier caso yo le diré lo que valoraría

la estabilidad que garantiza un presupuesto aprobado segundo la decisión de presentar en bruselas un plan presupuestario asumiendo la aplicación de los requerimientos de déficit de deuda de regla de gasto europeos y le recuerdo la advertencia de la unión europea al gobierno español

por los incumplimientos en el proyecto presupuestario del año dos mil dieciséis tercero también valoraría la continuidad de las partidas en infraestructuras en inversiones y líneas de apoyo económico a desarrollar en euskadi y cuarto también valoraría el cumplimiento de los compromisos en relación a la garantía de los servicios sociales el incremento del salario mínimo la inversión

está bien en todo caso hablar sobre los presupuestos generales del estado pero nuestra responsabilidad está aquí y la pregunta que tenemos que plantearnos es cómo pueden mejorar los presupuestos del gobierno vasco del gobierno vasco la vida

esta es la pregunta a la que todos los grupos parlamentarios incluido el suyo deberían responder ante la ciudadanía vasca y le pediría que no se autoexcluya

gracias señor lehendakari antiguamente preguntábamos nosotros los de la oposición pero ahora me pregunta usted a mí y la verdad que lo tengo por una consideración particular que tiene hacia mi persona y que seguramente

no merece sí le voy a responder a una de sus afirmaciones la primera razón por la cual usted considera razonable

ha dicho que es que garantiza la estabilidad política una semana la última vez garantizó la estabilidad política

tampoco sé qué estabilidad política se puede conseguir en el conjunto de españa cuando para aprobar los presupuestos

estabilidad política extraños socios todos ustedes tienen que votar esos presupuestos para que salgan adelante

en los hombros de bildu esa es la circunstancia y por tanto creo sí que hacemos bien en hablar de política pero usted me pregunta a mí por lo que ocurre en euskadi

y quiero tenerles todavía por personas serias y al señor azpiazu por una persona también seria y responsable que antes de aprobar unos presupuestos de fantasía con podemos o unos presupuestos ya no tengo calificativos con bildu pues preferían ustedes una situación de prórroga incluso le dije oiga yo le ayudo

pero están ustedes el problema se lo voy a decir muy seriamente no es que como le ha reprochado al señor lander martínez no vayan a encontrar la reciprocidad por parte de podemos en el país vasco fíjese antes tenía usted eso reciprocidad

porque en madrid el paso lo marca podemos el problema es la relación con bildu

y que las señales son siempre en la misma dirección bildu vive en un callejón y usted va al callejón

pero va constantemente con el pacto en materia de autogobierno esa es la estrategia política ayer en las escuelas quieren mandar qué

van a marcar en todo el paso en el futuro de la convivencia de los vascos en lo que explicamos de lo que pasó aquí

traje una proposición a la cámara para retrotraer los trabajos de la ponencia dé marcha atrás y en lo demás ya no le pido que retire los vídeos que ayer fueron polémica le pido que retire

galdera da cómo valora para el país vasco el borrador de los presupuestos generales del estado recientemente aprobado señor alonso mire creo que tiene un problema de audición o de comprensión porque

o en todo caso también tiene un problema de un carácter exclusivista usted ha dicho que yo le he preguntado

lo que he hecho es lo que deberíamos preguntarnos he dicho lo que deberíamos preguntarnos todos en general segundo

tercero usted ha hecho mención a la estabilidad política y yo no he hablado de estabilidad política de estabilidad en todo caso

ante bruselas y considero responsable que se muestre una disposición a la negociación con otros grupos para su aprobación exactamente lo mismo que hicimos aquí de común acuerdo el año pasado y el anterior con un resultado positivo para la ciudadanía señor alonso y no entiendo que se autodescarte cuando hemos cumplido los acuerdos alcanzados

invertimos más generamos crecimiento económico y se crea empleo precisamente para lograr esto acordamos el presupuesto y no entiendo que se niegue ahora a negociar un presupuesto que en todo caso será mejor que el anterior y que se niegue en base a lo que años atrás ya decíamos aquí algunos el raca raca y algunos décimos el erre que erre en relación a la política fiscal por ejemplo

la tenemos aquí y la hemos aprobado con ustedes señor alonso mire la política fiscal vasca es más atractiva para la inversión según todos los analistas según lo que se plantea en el proyecto de presupuestos generales del estado

y le hago esta referencia por lo que supone también de lo que ha sido el acuerdo entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista y el partido popular insisto
no se autodescarte de una responsabilidad que también le afecta a usted eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua

no es momento para sentarnos a hablar de transferir absolutamente nada del sistema de la seguridad social

ni siquiera para sentarse a hablar bilateraltasuna eta borondatea eta

no no no es momento ni para sentarse a hablar eta kazetariak insistitzen dio pero esta transferencia es una línea roja para el pnv

eta erantzuten du pues el pnv deberá decidir qué es lo que hace y esa es nuestra pregunta de hoy

qué es lo que va a hacer el pnv o en este caso el gobierno vasco

para que la transferencia de la seguridad social sea transferida ya

nos comprometemos a trabajar para que en la agenda de relaciones bilaterales a entablar con el gobierno central se reserve un lugar prioritario

de las transferencias que el gobierno vasco identifique como pendientes de realización otorgando un lugar destacado a las siguientes a centros penitenciarios b gestión del régimen económico de la seguridad social en los términos de la disposición transitoria quinta del estatuto

zerorrek esaten zenuen el modelo de estado ha fracasado y está roto hori da arazoa hori da diagnostikoa

alegia el modelo de estado ha fracasado y está roto ez dugu ulertzen praxia

reitero por lo tanto que una sentencia de mil novecientos noventa del propio tribunal constitucional advierte literalmente lo siguiente y dice así el gobierno del estado es el máximo responsable de la finalización efectiva del reparto de competencias es el gobierno del estado quien debe extremar el celo por llegar a acuerdos en la comisión mixta

política también se ha puesto encima de la mesa en las cortes generales la incorporación al ordenamiento jurídico de mecanismos que permitan desbloquear el proceso de traspasos de servicios

y una vez hayamos obtenido la aquiescencia política necesaria plantearemos el modo de desarrollar con la máxima eficacia la asunción y la puesta en práctica

y construiremos las estructuras necesarias para poder llevar una gestión compleja y difícil de cuadrar en lo económico y lo haremos en cualquier caso porque esta es una prioridad

y bienestar social en euskadi tal y como hemos declarado siempre y como demostramos los años dos mil nueve y los años dos mil diez en las negociaciones con el gobierno de rodríguez zapatero vamos a enfocar la transferencia

el objetivo es dar los pasos necesarios para poder asumir todas las funciones y además poder ir diseñando con racionalidad nuestras estructuras de gestión

en esta línea planteamos entonces y reiteramos ahora que resultaría aconsejable completar en primer lugar el traspaso de algunas materias que complementan el sistema y que pueden considerarse de manera autónoma y sucesiva todo ello a fin de ir ganando en eficacia creemos por lo tanto factible afrontar por este orden las transferencias parciales de seguro escolar la gestión de las mutuas colaboradoras con la seguridad social

como sistema específico de atención de las prestaciones por desempleo así hasta asumir el grueso de las funciones propias de la gestión que desarrollan

así como en su caso la propia tesorería bukatzeko urruzuno jauna

venga respaldada por un amplio consenso de esta cámara como lo ha sido también en la referencia que usted ha hecho a los acuerdos que se han alcanzado en este parlamento

egoki den egutegia ere ondorengo negoziaketarako y hoy podemos recordar además de los dos pronunciamientos o los dos pronunciamientos más recientes

de este año en este parlamento vasco estos acuerdos fueron remitidos por mi parte

al presidente del gobierno entonces señor rajoy el acuerdo de este parlamento

instando a dar respuestas o dar respuesta en tiempo y forma a un acuerdo ampliamente respaldado por este parlamento erabaki bi hauen jatorrian

nuestro objetivo es contar con un programa y un calendario de transparencias en el plazo aprobado por este parlamento

abordar el proceso de negociación con una actitud de respeto de confianza y de flexibilidad y nuestra voluntad política es lograr un cambio de actitud positivo

política pendiente desde hace treinta y nueve años esperamos contar para ello también con el firme respaldo de esta cámara y del conjunto de la sociedad vasca eskerrik asko

el pasado diez de octubre tuvo lugar la comisión de salud para que el señor diera cuentas de la investigación llevada a cabo por osakidetza en relación al fraude

a las diferentes actas de los tribunales y expedientes informativos de osakidetza quedó constancia

además se ha ocultado pruebas que demostrarían el fraude no depurando responsabilidades sobre lo sucedido y sin embargo castigando doblemente a las personas opositoras a repetir de nuevo los exámenes y de nuevo sin ninguna garantía a elkarrekin podemos le parece extremadamente grave por lo que el miércoles pasado solicitamos el cese del consejero cese que no se ha producido qué motivos encuentra el señor lehendakari para no cesar al consejero de salud tras su irresponsable gestión en la crisis de las ope

de la crisis de la oferta pública de empleo está siendo rápida responsable y transparente

señor urkullu de nuevo alguien de su partido le desautoriza

mire yo entiendo lo complejo de gobernar en mayoría menos uno y que una crisis de gobierno no es lo mejor en plenos presupuestos y a las puertas de una elecciones pero es que mientras usted hablaba de transparencia en la investigación del fraude de las ope de osakidetza su consejero el señor darpón se gastaba catorce mil novecientos noventa y nueve euros más iva en un informe de apellido oviedo

hemos tenido que pedir toda la información necesaria para llevar a cabo nuestra labor de oposición y se nos ha dificultado en exceso y hasta el punto de mostrarnos informes con párrafos tapados ocultos

a una investigación que no ha tenido por objeto nada que no fuera ocultar

una investigación que ha dejado fuera un montón de especialidades con el mismo patrón que las investigadas una investigación que no ha resuelto nada ni ha depurado ningún tipo de responsabilidad

ha consistido la investigación llevada a cabo por osakidetza hay un máximo responsable

usted sabe que su consejero no ha sabido gestionar esta crisis pero es que además el veinticuatro de abril de este mismo año un mes antes de la celebración del examen de cardiología

que las filtraciones eran moneda corriente en este tipo de exámenes por parte de miembros del tribunal

y cito literalmente tengo razones fundadas para creer que parte del tribunal de la ope de la que formamos parte

con vistas a una filtración selectiva a las tres semanas se celebró el examen veintidós plazas y veintidós exámenes con una nota perfecta

usted pidió perdón a las víctimas de la estafa el pasado veinte de septiembre

les condena a repetir el examen con el mismo tribunal lehendakari está a tiempo de pagar esta deuda

no garantizó la igualdad de oportunidades no pierda esa oportunidad porque osakidetza efectivamente el tercio del total de su presupuesto

y más sosegado alguien de mi partido me ha desautorizado ya me dirá alguien quién me ha desautorizado

la estafa la ha dicho usted y usted tendrá que probarlo en su caso si quiere mire el consejero

ha mostrado su compromiso desde el primer momento ha solicitado un estudio psicométrico independiente para todas las pruebas realizadas y a la vista de los resultados se ha impulsado la apertura de los ocho expediente informativos

han sido los propios tribunales afectados los que en virtud de su autonomía los que en virtud de su autonomía han decidido repetir las pruebas en tres categorías y dar continuidad a las restantes ha garantizado que la ope culmine con plenas garantías de igualdad de oportunidades ha comprometido llegar hasta el final en la investigación y ha informado con transparencia

a la comisión de seguimiento a los grupos parlamentarios señora macazaga y al ararteko enviando también los expedientes informativos por iniciativa propia a la fiscalía si usted no llega a todo esto señora macazaga estamos en un mundo

está elaborando el consejero también las propuestas de mejora tal y como ha solicitado este parlamento y ha actuado con responsabilidad con celeridad y con prudencia

señora macazaga usted cuenta con toda la información estamos haciendo lo que de vemos hacer ofreciendo toda la información y respetando la presunción de inocencia de las personas esto es una gestión responsable mire la responsabilidad del consejero el departamento

pública de empleo con todas las garantías de igualdad de oportunidades esa es la responsabilidad y así lo está haciendo con dedicación absoluta y ofreciendo una información detallada y completa y en lo que se refiere a la gestión además

continua ofreciendo una atención de calidad mejora sus equipos con una inversión adicional de quince millónes garantiza la interoperabilidad de la receta electrónica

aprueba la estrategia sociosanitaria y elabora la de atención primario

completa los servicios del hospital de urduliz y el lunes abre el nuevo hospital de eibar entre otras cosas de osakidetza y del departamento de salud y su gestión

el resultado lo ha publicado la federación de asociaciones para la defensa de la sanidad pública del estado el servicio sanitario público vasco es el mejor de todas las comunidades

responsable del servicio vasco de salud que cuenta con el reconocimiento de la sociedad del gobierno y del mío propio así como el reconocimiento al consejero

la sentencia del tribunal constitucional del pasado diecinueve de septiembre sobre nuestra ley de vivienda de dos mil quince por cierto una sentencia adoptada por unanimidad

y esta convalidación nos va a permitir desarrollar la norma en toda su extensión sustantiva como hemos indicado en otras ocasiones el contenido de la ley

mandatos y previsiones que requieren de posteriores desarrollos reglamentarios internamente los hemos agrupado en alrededor de veintiuno desarrollos

pero creo que esta pausa es comprensible porque se debe a dos variables que nos hemos encontrado en el camino en primer lugar las incertidumbres amenazantes que se cernían sobre la ley debido al recurso ante el tribunal constitucional que presentó en dos mil dieciséis el gobierno del partido popular que se han despejado hace solo escasos días y de forma positiva como he indicado

de una ley tienen sus propios procedimientos administrativos de consulta y tramitación que no son precisamente breves además en muchos aspectos no solo hablamos de meras normas sino de auténticos cambios de sistema y de modelo

y no solo normativos se han desarrollado ya mediante decreto dos reglamentos muy importantes como fue el

en la anterior legislatura y ya en esta el que regula la inspección técnica de edificios

aprobamos también el año pasado el decreto instrumental sobre financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda para dos mil diecisiete

vamos a aprobar otro decreto instrumental sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda que va a dar soporte a este apartado financiero hasta el dos mil veinte es decir para toda la legislatura este decreto va con dos instrumentos adicionales asociados como son el convenio financiero con entidades de crédito

que se extenderá hasta dos mil veintitrés y que enlaza con las actuaciones intensivas en materia de rehabilitación contenidas

el programa operativo feder dos mil catorce dos mil veinte la vivienda ha conseguido por primera vez entrar en la composición de esos fondos estructurales europeos y estamos consiguiendo

en esta materia por el departamento en el dos mil diecinueve vamos a aprobar dos reglamentos absolutamente decisivos para la ley de vivienda

deshabitadas en lo que se refiere al futuro decreto del derecho subjetivo a la vivienda lo que usted ha dicho

pero debo matizar que ahora mismo el alcance del derecho subjetivo está siendo ya garantizado en todos sus extremos porque en dos mil dieciocho

los tres pasos sucesivos de incorporación al derecho subjetivo que contemplaba la disposición transitoria cuarta de la ley de vivienda por lo que puede afirmarse

como bien sabe y con los resultados que venimos ofreciendo regularmente

a treinta y uno de septiembre de este año se habían recibido cinco mil cuatrocientos cuarenta y uno solicitudes de derecho subjetivo a la vivienda y llevamos reconocidos tres mil setecientos setenta y nueve derechos a su vez

están siendo satisfechas bien desde el propio departamento de vivienda mediante la prestación económica de vivienda vinculada al derecho subjetivo

por lanbide a través de la prestación complementaria de vivienda en este caso según datos referidos a agosto

las prestaciones abonadas y quiero insistir en esta idea

o no del decreto que desarrolla el derecho subjetivo de vivienda los derechos que reconoce la ley se están materializando en todos sus términos sin ningún menoscabo a la ciudadanía

ahora bien el nuevo decreto del derecho subjetivo a la vivienda lleva aparejado la automática extinción de la prestación complementaria de vivienda y su integración en la política de vivienda y para ello es preciso crear una nueva estructura de medios

que nos permitan gestionar íntegramente el derecho a acceso a la vivienda en los términos de la ley de dos mil quince y garantizar el plan de traspaso y convergencia

de vivienda se trata de un proceso complejo difícil en el que tenemos una prioridad absoluta que ninguna persona portadora de derechos

por el transito administrativo entre ambos sistemas de hecho

a asegurar que en términos efectivos que nadie se quede en el camino en este cambio estructural que tenemos que abordar

del derecho subjetivo a la vivienda están cerrados tenemos avanzado la literatura del decreto pero los recursos asociados

aún se encuentran en proceso de configuración todos los factores que intervienen en este cambio estructural

confluirán y verán la luz como le decía a lo largo del año dos mil diecinueve

de vivienda en lo que se refiere al decreto de vivienda deshabitada disponemos ya de un texto inicial completo

la previsión es que pueda aprobarse en el segundo semestre del próximo año pero de la misma forma que hemos aprovechado la espera de la sentencia del tribunal constitucional para avanzar en su redacción

para asegurar que el decreto pueda tener eficacia casi desde el momento

en este ámbito es fundamental acertar y conseguir una plena sintonía con los ayuntamientos que son las instituciones que deben utilizar en primera instancia las herramientas de intervención

para informar a los municipios a través de eudel de las tripas del decreto y también para ayudarles a preparar suplicación como se ha hecho

la experiencia que acumula el departamento en la inspección de vivienda que utiliza en la práctica los mismos medios de prueba recogidos en la ley para determinar si una vivienda está deshabitada

a servir también en este asunto ha hecho usted referencia a

de destino de recursos en más de un ochenta por ciento a las políticas de vivienda

al alquiler compromisos que se están cumpliendo por este departamento que se recogen también

y que a partir del dos mil veinte esos recursos exceptuando a los que se destinan a la rehabilitación tendrán que ser del

y en cuanto a la fusión en un organismo autónomo de las sociedades públicas del área de vivienda consideramos y se lo hemos dicho en otras ocasiones que ciertamente

que nos consumen las capacidades y los recursos usted sabe que históricamente se ha venido produciendo ya una concentración en las sociedades de vivienda de hecho

también se produjo la integración en visesa de orubide a día de hoy tanto visesa como alokabide están perfectamente alineadas con la política que marca la y funciona a la práctica como dos áreas de la misma una dedicada a la gestión del alquiler

además el que diéramos el paso de hacer el ente público supondría que tendríamos que

importante cantidad de dinero que yo creo que más prioritario destinar a las políticas reales de alquiler bien
tengo más líneas de actuación que le comentaré pero el tiempo se agota y en mi siguiente turno ya seguiremos hablando eskerrik asko arriola jauna amaitu zaizu denbora

señora otamendi efectivamente el parlamento nos pidió que avanzáramos

sin esperar a la sentencia del tribunal constitucional y es lo que hemos hecho es lo que hemos hecho y a partir de la sentencia una vez que conocemos ya y tenemos seguridad jurídica iniciamos conversaciones y contactos con todos los grupos de esta cámara lo vamos a hacer con eudel

estamos a diecinueve de octubre y el objetivo es que

y usted sabe lo que tarda aquí aprobarse un decreto en esta administración

le puedo decir que a partir del dos mil veinte no se iniciarán nuevas viviendas de promoción pública destinadas a la venta este es el compromiso y esto es

que puedo garantizarle desde la tribuna en cumplimiento de la ley de vivienda

en el año dos mil diecinueve también van a entrar en vigor otras normas trascendentes para la política de vivienda una va a venir de la mano de los nuevos sistemas de ayuda a la rehabilitación de viviendas y edificios accesibilidad y eficiencia energética que se van a integrar en un único sistema

por reforzar la política de rehabilitación y dentro de ella

vinculándolas a su previa reforma estructural así como un plan especial de accesibilidad muy potente enfocado para las personas mayores de sesenta y cinco años

va a consistir en la puesta en marcha de nuevos programas de fomento del arrendamiento para lograr que económicamente sea factible la intervención privada mediante colaboración público privada

a precios asequibles el departamento y visesa venimos cumpliendo y cumpliremos los objetivos

en esta causa también publicaremos otro decreto instrumental relativo en este caso a la modernización del programa asap aumentando sus escalas de precios de renta y la potencia del apoyo público aunque siempre con diferenciales importantes con respecto al programa

en dos mil veinte queremos aprobar el nuevo decreto de etxebide con la salvedad de que los aspectos referidos a la cohesión social

de este próximo año asimismo se acometerá en dos mil veinte la nueva regulación reglamentaria

capítulo séptimo y el decreto que desarrollará el patrimonio público de suelo

porque no ha variado desde el año dos mil diez y entendemos que ha llegado la hora de plasmar

los múltiples cambios de contexto y estructurales generados en esta década como ve señora otamendi aunque cuesta sacar adelante el despliegue de la ley de vivienda

dos mil veinte y en esta sede parlamentaria afirmé que la visión y el propósito del departamento era tener encauzado en tres años el desarrollo de la ley de vivienda creo que se está cumpliendo con esta programación que no se limita al importante trabajo normativo que se está desarrollando porque responder a los requerimientos de la

los recursos económicos necesarios y aplicar un modelo de gestión eficiente a la ciudadanía y a las demás instituciones solo así seremos capaces de sentar las bases de una nueva política de vivienda sostenible en el largo plazo que atienda de verdad

y a las necesidades de las personas y en esa tarea estamos

izendatzeko eukaliptoa espezie inbasore exotiko bezala la interpelación que le hacemos es clara el día de hoy creemos que los problemas que crea el eucalipto que son graves porque altera el suelo porque

porque provoca el desplazamiento de especies autóctonas y coloniza permite colonizar a otras especies no autóctonas y además porque se expande

los problemas como digo del eucalipto el temor que tiene nuestro grupo es que con las enfermedades del pino con la enfermedad de pino sean utilizados para plantar más eucalyptus y que por lo tanto el problema se incremente la crisis del pino lo que va provocar es por un lado que haya más espacios

que en los terrenos privados se opte por sustituir una especie de crecimiento rápido como el pino

estas soluciones que posiblemente que es nuestro miedo se puedan adoptar no son una solución desde el punto de vista de la gestión forestal pero sí que son un recurso digamos económico fácil de conseguir un retorno de la inversión rápido pero a la vez son una amenaza importante para desde el punto de vista ecológico y entonces

asociados al eucalipto que los tienen otras regiones en mucha mayor medida

no vengan aquí a euskadi y el gobierno vasco tiene una competencia tiene una competencia en la materia que puede utilizar y es la de inscribir el eucalipto en el catálogo vasco exóticas existe una unanimidad científica en torno a los riesgos a los daños que puede provocar el eucalipto

ha dicho en un informe emitido el uno de diciembre de dos mil diecisiete que el eucalipto tiene un carácter invasor por un lado

hay que extremar la precaución con nuevas introducciones y plantaciones así como llevar a cabo medidas de erradicación siempre que se observe naturalización de cualquier especie de eucalyptus en nuestro territorio este comité científico se refiere al estado español pero

estas recomendaciones son perfectamente ampliables al territorio vasco entonces el gobierno vasco tiene la posibilidad de impedir que esto suceda de impedir que el eucalipto progrese en nuestro territorio progrese en las políticas

por un lado ustedes como administración pueden proponer que se incluya el eucalipto en el catálogo estatal de especies invasoras y por otro lado pueden inscribirlo en el catálogo vasco de especies invasoras

y la pregunta es clara y no voy a agotar el tiempo en formularla

utilizar alguna de estas vías para evitar los problemas que vienen asociados al eucalipto eskerrik asko becerra jauna erantzuteko

gracias señora presidenta señor becerra en primer lugar me gustaría matizar la justificación de la pregunta ya que presenta como un hecho de validez incontestable lo que es una recomendación de un comité porque es cierto

entonces ministerio de agricultura y pesca y alimentación y medio ambiente hoy ministerios para la transición ecológica

el carácter invasor de las distintas variedades

a todas las especies de eucalyptus cuyo destino sea la explotación forestal debido al alto riesgo de invasión por estas especies a consecuencia de sus características biológicas fisiológicas y ecológicas pero también es conveniente precisar que este dictamen fue analizado como una aportación más dentro del procedimiento

un procedimiento que finalizó también hay que decirlo con la desestimación de la solicitud de inclusión del eucalipto en el catálogo español de especies exóticas no invasoras la desestimación ha sido recurrida por el concello de teo

pero en la tramitación de la solicitud la subdirección general de política forestal del propio ministerio emitió otro informe denunciaba una actitud tendenciosa por parte del comité científico en orden a emitir un juicio de valor premeditado en cuanto al carácter invasor de estas especies

y políticas y aportó

de la universidad politécnica de madrid que sostiene que las plantaciones de eucalipto juegan un rol fundamental en el desarrollo rural de la cornisa cantábrica

a una estricta regulación normativa para su plantación no pudiendo ser consideradas como especie invasora al no existir ni base ni consenso científico para su declaración

sus plantaciones con esto señor becerra no pretendo prejuzgar nada ni aliviarme

opinión unánime y que para abordarla hay que tener en cuenta diversas circunstancias

sobre el problema general de las especies exóticas invasoras hay que indicar que el reglamento europeo de dos mil catorce sobre la prevención de la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras define como especie exótica cualquier ejemplar vivo de una especie o subespecie inferior de animales plantas hongos

natural por su parte la ley estatal de patrimonio natural y biodiversidad

en único sistema o hábito natural o seminatural y que son un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa ya sea por su comportamiento invasor

genética es bien conocido y aceptado internacionalmente por expertos

que las invasiones biológicas y las especies exóticas invasoras representan una de las principales amenazas para la biodiversidad y los servicios asociados de los ecosistemas igualmente existe una amplia comprensión de que los riesgos que

intensificar debido al aumento del comercio global el transporte el turismo y el cambio climático

incluye efectos graves sobre las especies autóctonas

fomenta la depredación la competencia la trasmisión de enfermedades la sustitución de especies autóctonas en una proporción considerable de su área de distribución y generan efectos genéticos

por otro lado las especies exóticas invasoras también pueden repercutir adversamente en la salud humana y en la economía ahora bien desde el punto de vista normativo se han ido promulgando normas importantes a diferentes niveles administrativos

incluye un capítulo dedicado a la prevención y control de las especies exóticas invasoras a través de la creación del catálogo español de especies exóticas invasoras en el que se incluyen cuando existe información técnica o científica que así lo aconseje todas aquellas especies y subespecies que constituyen una amenaza grave para las especies autóctonas los hábitat los ecosistemas o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural la determinación de estas especies se aprobó en primera instancia por medio de un real decreto de noviembre de dos mil once con el que se regula el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras

invasor que incluía aunque solo por el ámbito de canarias dos especies de eucalyptus eucalyptus camaldunensis y eucalyptus globulus

sin embargo este real decreto de dos mil once fue anulado por los tribunales

por el real decreto seiscientos treinta barra dos mil trece de dos de agosto por el que se regula el catálogo español de especies exóticas invasoras y se da la circunstancia de que en este decreto desaparece el listado de especies exóticas como potencial invasor y por tanto

posteriormente a finales de dos mil catorce se aprobó para toda la unión europea el reglamento número

sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras en él se prevé

cuya primera versión se aprobó a mediados de dos mil dieciséis pues bien este listado tampoco incluye ninguna de las especies del género eucaliptos

ni la ley de conservación de la naturaleza al país vasco de mil novecientos noventa y cuatro

incluyen referencias explicitas a las especies exóticas invasoras lo único que se dice es que la actuación de las administraciones públicas vascas en favor de la presentación de la preservación de la diversidad genética del patrimonio natural se basará principalmente

entre otros en el siguiente criterio ponderar la introducción y proliferación de especies subespecies o razas geográficas distintas

y evitarlas en la medida que puedan competir con estas alterar su pureza genética

ecológicos ahora bien sí le anticipo que en el anteproyecto de ley de conservación de patrimonio natural de euskadi

de respuesta a alegaciones se dedica un título a la protección de especies silvestres de fauna y flora y un articulado se prevé la creación del catálogo vasco de especies exóticas invasoras que pueda incluir

así como las medidas para prevenir su arraigo controlar y hacer el seguimiento de su presencia y si es posible para su erradicación pero todo eso por supuesto habrá que hacerlo en consonancia con la normativa que exista en el marco europeo porque no somos una isla y además teniendo en cuenta las evidencia científicas

señor arriola a ver para actuar en este tema ustedes necesitan tres cosas una

dos evidencias científicas y tres voluntad política instrumentos jurídicos tienen no es necesario esperar a su proyecto de ley

de biodiversidad la ley estatal dice en su artículo sesenta y cuatro punto seis las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales podrán establecer catálogos de especies exóticas invasoras

es decir ustedes tienen a día de hoy herramientas jurídicas suficientes para actuar la siguiente cuestión es la de las evidencias científicas y ahí me ha preocupado

el comité científico designado por el ministerio con diecinueve integrantes todos ellos profesores universitarios doctores o doctoras y absolutamente expertos en la materia haya dado una opinión política me preocupa porque diecinueve opiniones de las cuales una de ellas es el experto designado por euskadi que trabaja en la sociedad pública ihobe yo quiero que usted me diga ese experto de la sociedad pública ihobe ha dado una opinión política o es un experto en la materia de verdad por lo tanto yo creo que cuestionar

de diecinueve expertos de un comité científico oficialmente designado por un ministerio que cuando dice algo que al ministerio no le gusta el ministerio encarga un contrainforme

de vista humilde yo quiero que usted me confirme si la persona la persona designada por euskadi para estar en ese comité ha dado una opinión

la junta de andalucía que tiene su misma opinión política ha designado

y está sustituyendo el eucalipto en todos los espacios naturales públicos de andalucía y yo quisiera que me diga

a la lucha contra el eucalipto como especie invasora esas tres cuestiones me tiene que responder si tiene instrumentos jurídicos y los van a utilizar si le parece que la opinión

y si a usted le parece que la junta de andalucía está actuando mal y que por lo tanto debería de plegarse a otros intereses que no sean los de la protección de la naturaleza nada más gracias

gracias señora presidenta señor becerra yo hablo despacio hoy para que se me entienda porque además si hablo rápido igual

pero cuando hablo despacio suelo por lo menos pensar que me entienden cuando

y en cuanto a la referencia que me dice usted si yo considero que es una opinión política o dejo de considerar porque

lo que plantean los expertos en cuanto al eucalyptus le voy a volver a leer el párrafo a ver si esta vez con la segunda lectura se le queda a usted más grabado lo que quería decir

emitió otro informe en el que denunciaba una actitud tendenciosa por parte del comité científico en orden a emitir un juicio de valor en cuanto al carácter invasor de estas especies presuntamente basado

y políticas le queda claro yo no he manifestado en esta tribuna que mi opinión sea esa estoy

que esta cuestión es una cuestión en la que no hay unanimidad y que hay opiniones científicas también encontradas

a un informe experto a continuación de este párrafo bien señor becerra

que esta interpelación la ha traído primero para hacer una moción aquí son

precisamente para hacer la moción no como consecuencia de la misma ha traído aquí esta interpelación

por la infección conocida como banda marrón y sus efectos en el sector forestal vasco y es cierto que este sector los últimos años

mayor plantación de eucalipto aunque hay que decir la verdad

en euskadi de toda la superficie forestal asciende a un total de dieciocho mil ciento noventa y cuatro hectáreas

en euskadi sin embargo y no siendo ajenos a las implicaciones ambientales y de otro tipo que tiene el asunto creemos que el problema no se resuelve por la vía expedita de declarar las distintas variedades de eucalyptus como especies exóticas o invasoras en el territorio de euskadi y usted lo sabe perfectamente

no existe en estos momentos en segundo lugar cualquier decisión debe abordarse con el mayor rigor científico y técnico apoyándose en pruebas científicas que avalen el carácter invasor

en el territorio de la comunidad en tercer lugar habrá que contar con el conjunto de las administraciones públicas concernidas y también

y el forestal y por supuesto habrá que tener en cuenta las implicaciones ambientales sociales y económicas ponderando los pasos plazos medidas alternativas medidas incluso compensación etcétera nuestro departamento

y su aprovechamiento económico sostenible que es garantía para su adecuada conservación así lo estamos haciendo

y su vulnerabilidad concretamente en la reserva de la biosfera de urdaibai

y robles en este sentido estamos tramitando un decreto por el que textualmente

y a su gestión medioambiental adecuada por medio de acuerdos de custodia este decreto

pretende impulsar la sustitución progresiva de especies forestales alóctonas ajenas a

por otros autóctonas y más acordes con las características ambientales de nuestro territorio compensando a los titulares de

por la reducción de rentabilidad del cambio y también vamos a dar cobertura de apoyo a los acuerdos de custodia con entidades conservacionistas

son perfectamente trasladables a otros ámbitos más amplios y ayudarán a algo en lo que usted y yo estamos de acuerdo
una gestión forestal más sostenible y en sintonía con otros ecosistemas muchas gracias eskerrik asko arriola jauna

la encuesta de necesidades y demandantes de vivienda dice que la sociedad vasca

viviendas para cubrir la necesidad de acceso a la primera vivienda y otras cincuenta mil para cambiar de vivienda habitual además

garatu behar ditugu y hoy hablamos de sentencias ha hablado antes hablamos de leyes de decretos pero

vasca de la necesidad de tener una vivienda digna y una vivienda digna

de vivienda estamos hablando de derechos derechos que sirven para satisfacer o no si se cumplen o no los sueños de nuestra

es que tenemos una ley una ley que no es nuestra ley pero que es la ley que se aprobó y que tiene instrumentos potentes

lento y en un primer momento también por una sentencia

y también con instrumentos que no son adecuados para satisfacer con garantías el derecho a la vivienda porque

y se está convirtiendo en la norma y porque tampoco con doscientos cincuenta euros vamos a satisfacer necesidad teniendo en cuenta además que entre el año dos mil trece y dos mil dieciocho el precio del alquiler la media en euskadi ha subido un veinte por ciento y en solo un año en bizkaia el cinco por ciento y en gipuzkoa el veintitrés por ciento

la ley actual tiene herramientas que tienen que ser desarrolladas porque si no no sirve como el registro de viviendas vacías el cobro del canon el alquiler forzoso

herramientas que sirvan para movilizar el parque de vivienda tenemos que desarrollar con urgencia esta ley dado también la problemática

fuera la ley hay ciertas ambigüedades que hay que aclarar que hay que desarrollar

temas que quedan en competencias de los ayuntamientos otros del gobierno vasco algunos quedan en

desarrollar con garantías ese aspecto esos aspectos

una proposición no de ley que se aprobó en este pleno que instaba a quedar en el menor tiempo posible

vale junio julio cuatro de julio dos mil dieciocho presentación del plan director propuestas de resolución consensuamos

que decía que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a definir los procedimientos necesarios y realizar todas las acciones precisas para que en el momento en el que el tribunal constitucional levante la suspensión vigente se pueda poner en marcha el registro de viviendas deshabitadas nadie está diciendo

del conocimiento de la sentencia se pusiera en marcha pero tampoco creo que los plazos se tengan que ir hasta finales de dos mil diecinueve porque se podía haber hecho un trabajo

como hemos dicho y como se ha dicho anteriormente hace pública la

nadie dice lo contrario se valida la definición de la vivienda deshabitada como incumplimiento de su función social pero en una comparecencia de su

en cuanto a las acciones que va a realizar el gobierno vasco en esta materia y por eso hacemos esta interpelación en esa comparecencia se afirmó y bueno lo hemos oído también en el día de hoy que el desarrollo reglamentario va a culminar en el segundo semestre de dos mil diecinueve

para cuando esté la sentencia publicada ningún grupo de esta cámara creo que va ya lo he dicho creo que va a pedir que se haga de forma inmediata al minuto siguiente a la publicación de de la sentencia pero eso no justifica

ese consenso en el monográfico de vivienda es que fuera lo más rápido posible y un año o más de un año no parece que sea lo más rápido posible y tenemos el precedente además del decreto del derecho subjetivo de la vivienda que se está

y no sabemos qué pasa la sociedad vasca hizo alegaciones están ahí no sabemos lo que va

aplikazioa si hablamos del tema de la vivienda desocupada hay distintas leyes en el estado español la ley vasca se queda un poco en la mitad en el medio de las leyes que se han ido

los ayuntamientos y el gobierno vasco pero en la comparecencia igual que con los plazos nos quedamos también en la comparecencia que hicieron ante los medios de comunicación después de la sentencia nos quedan algunas dudas

esta interpelación porque a pesar que se dice que se considera que habrá ayuntamientos que actuarán dentro de las propias competencias municipales después indica que para aplicar el conjunto de medidas de la ley hay que esperar al desarrollo reglamentario del procedimiento de creación de vivienda deshabitada algo que

de un año entonces de esto también resulta que no nos queda claro al menos a nosotros que si los ayuntamientos pueden optar por no desarrollar ninguna reglamentación en absoluto

y así esperar a que el gobierno actúe en los

si van a tener que esperar a esa reglamentación del gobierno o no y luego la regulación del canon se entiende que se puede hacer por ordenanza municipal igual que se hace con el recargo

de lo que ya viene establecido en la ley pero no tenemos claro si desde el gobierno vasco se va a realizar algún tipo de normativa también de rango autonómico y en cuanto al alquiler forzoso que es otro de los aspectos que hay que

de vivienda pero no sabemos si es el gobierno vasco el que tiene que desarrollar cómo se va a hacer eso o la declaración esa forzosa la tienen que hacer los ayuntamientos tienen que tomar esa iniciativa dentro de las propias competencias municipales en materia de expropiación

la interpelación estas indefiniciones que algunas venían arrastradas de la propia ley pero también en el propio desarrollo reglamentario de la misma no nos queda claro después también

constitucional y después de esa rueda

se interpela para saber la previsión del departamento para aplicar todas estas

gracias señora presidenta señor martínez es posible que recuerde que a primeros de abril de este año al responder a una

de eh bildu sobre la situación en que se encontraba el reglamento de viviendas deshabitadas

fechas inmediatas se había producido un hecho relevante sobre esta cuestión y me refería a la sentencia que con fecha de veintidós de febrero había dictado el tribunal constitucional

destaqué en esa contestación que el tribunal constitucional entendía que la comunidad foral de navarra era competente

la materia de vivienda y más precisamente en la definición de su función social mediante regulaciones orientadas a atender los intereses generales relacionados con la garantía

a una vivienda digna resultaban inconstitucionales sin embargo

forzosa en el caso de personas en especiales circunstancias de emergencia social

de desahucio por ejecución hipotecaria llevados a cabo por entidades financieras

concretamente la ley uno barra dos mil trece de catorce de mayo de medidas para reforzar la protección

o la creación del fondo social por consiguiente entendía el tribunal constitucional que estas medidas estatales ya imponían cargas a los acreedores hipotecarios

establecer medidas adicionales como las contempladas en la normativa navarra que el tribunal

de la competencia estatal en aquella misma respuesta por escrito señalé que en nuestro departamento creíamos que el fallo del tribunal constitucional

demasiado y expresamos nuestra confianza en que el tribunal constitucional reconocería al gobierno vasco la capacidad para determinar qué viviendas calificarse como deshabitadas en euskadi conforme a la definición legal de la ley vasca de vivienda y mediante el garantista procedimiento recogido en ella

una vez analizado el contenido de la citada sentencia habíamos procedido a poner en marcha internamente el desarrollo del reglamento que regulará el registro de viviendas deshabitadas con la intención de iniciar su tramitación como decreto

sí no empezamos a trabajar sobre el decreto

de la sentencia sobre la ley navarra reiniciamos el trabajo interno para tener elaborado un borrador que nos permitiera

poder iniciar también conversaciones con los grupos parlamentarios con eudel etcétera de forma que pudiéramos avanzar en la medida de lo posible el máximo

necesario para poder tener aprobado el proyecto de decreto y poder iniciar su tramitación procedimental de hecho estamos

que queremos iniciar la tramitación procedimental del decreto

estamos avanzando con paso decidido

sí que es cierto también en base a las resoluciones de esta cámara trabajar internamente para poder avanzar en lo que es el borrador del decreto recordará también que adelanté que en este tiempo de espera habíamos realizado los trabajos de campo en la encuesta sobre el uso de la vivienda que era una operación prevista en el último plan vasco de estadística hasta el dos mil quince esta encuesta estadística se denominó estadística sobre vivienda vacía

y determinar su uso según la vivienda o temporada y deshabitadas y dentro de estas últimas identificar

gestionables es una herramienta fundamental todo esto es decir se pretendía un doble objetivo por un lado se trataba de determinar la dimensión que tiene el fenómeno de la vivienda no principal en euskadi

y por otro lado disponer de una estimación del número de viviendas ocupadas y recabar información sobre su estado lugar de ubicación y sus características y de hecho

de lo que son los datos de esta encuesta que aplicando lo que son los parámetros

estaríamos hablando estimativamente de veinte mil ochocientos cuarenta

del parque de vivienda total de la comunidad que además de esto incluyendo aquellas viviendas que llevan desocupadas más de seis meses que son trece mil seiscientos veintiséis estaríamos hablando de un total de treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis viviendas que resultarían potencialmente

dinamización de la vivienda deshabitada en su conjunto un tres coma tres por ciento del parque de vivienda de euskadi hay que decir también

que por territorios las viviendas deshabitadas dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y seis están en bizkaia

y seis mil cuatrocientos en álava también hay que decir que en muchas ocasiones

más demanda por parte de la ciudadanía que son las ciudades grandes

de hecho si la media que tenemos de viviendas gestionables es de un tres coma tres por ciento del parque de vivienda

del uno coma ocho y donostia san sebastián concretamente un uno coma cuatro

y además hay que decir que el hecho de que estén deshabitadas no quiere decir que puedan ser habitadas inmediatamente

un treinta y siete coma siete por ciento podría habitarse de forma inmediata

necesitan una gran reforma en fin han transcurrido apenas seis meses de la respuesta a la que me hacía referencia

visto confirmadas positivamente por la fuerza de los hechos en primer lugar

de septiembre sobre la ley de vivienda adoptada hay que decirlo por unanimidad

y por tanto vamos a poder desarrollar la ley en toda su extensión sustantiva

que nos ha permitido tener una idea precisa como le he indicado

no principales en euskadi estimando el número de viviendas desocupadas y ofreciendo información sobre

y esta información es muy relevante para acertar el diseño de la política pública de vivienda además

como le he comentado con un borrador inicial del decreto

de la puesta en el mercado de la vivienda deshabitada porque el objetivo de la ley no es tanto

es que la vivienda deshabitada en este caso salga al mercado salga al mercado tanto de la venta como del alquiler y en la medida de lo posible también

en mayor medida las políticas de parque público de alquiler que realiza el gobierno vasco con sus programas de intermediación social y a partir de estos hitos y ya con

en nuestro departamento continuamos trabajando para aplicar todas las medidas contempladas en el capítulo noveno de la ley que dota a las administraciones competentes de los recursos necesarios para garantizar la función social de la vivienda y en ese sentido seguiremos trabajando para que esos objetivos podamos plasmarlos y tengamos las herramientas necesarias desde el punto de vista de desarrollo legislativo para que pueda ser una

el problema es que me he quedado igual o sea igual igual si la respuesta de bildu la conocíamos vamos a tener una reunión próximamente con el departamento

un reconocimiento eso sí que es un departamento que tenemos interlocución con los grupos que no es la tónica

en el gobierno pero también le tengo que reconocer cierta lentitud

en eso se explica bien pero cierta lentitud en el desarrollo de la ley y sobre todo indefinición y no es que la interpelación buscaba buscaba eso buscaba cierta definición del gobierno y yo pues bueno me he quedado igual entonces pues el compañero becerra antes le decía que

con la interpelación que tenía pues bueno yo pues sí después de la respuesta

lo registraremos en el registro porque no nos ha quedado clara ninguno de los elementos que

estaba por escrito ya lo sabemos pero esos procedimientos que

se han puesto en marcha si desde mi grupo parlamentario y otros grupo parlamentarios llegamos a un consenso para que diga que se va a poner en marcha el registro lo antes posible

en ningún momento le he dicho antes que pensábamos que iba a ser el lunes siguiente pero tampoco un año después

en este momento a más personal porque me tocó a mí gestionar ese debate

sí que puedo sentir una cosa es bueno no va a ser en un día pero tampoco en un año porque lo que he dicho al principio cualquier retraso injustificado en la aplicación en el desarrollo normativo reglamentario y presupuestario de la ley de vivienda tiene una repercusión directa

corriente de nuestro país en miles de personas que no ven satisfecho el derecho

uno de los elementos principales que posibilita tener una vida digna y eso es así puede ser palabra mayores

cualquier retraso retrasa la aplicación de ese derecho y cualquier también recorte encubierto a través de la aplicación masiva

también repercute directamente en la ciudadanía por tanto leyes similares han posibilitado por ejemplo en cataluña

que los ayuntamientos desde el primer día lo hagan pero la indefinición que tenemos aquí en euskadi va a posibilitar que bien por inseguridad jurídica o bien por falta de voluntad política los ayuntamientos desarrollen

papel del gobierno vasco además siendo usted de uno de los partidos que impulsó la ley de vivienda debería ser liderar ese proceso debería ser ordenar ese proceso debería ser hacerlo

de las celeridades posibles porque insisto de nuevo que eso repercute en la ciudadanía y repercute en la ciudadanía porque además a finales de año del año siguiente estaremos también además en año

va a ser capaz el gobierno vasco de cumplir también con el dos mil diecinueve

los plazos las preguntas que le iba a hacer también en la réplica son exactamente las mismas que

en la primera intervención que no han sido respondida porque los datos del informe aparte de por su rueda de prensa lo conocemos por parte del propio informe está bien que usted

en la cámara pero para eso no era la interpelación la interpelación era para una respuesta clara de qué va a hacer el gobierno qué va a ordenar el gobierno o qué no va a ordenar el gobierno y va a quedar al albur

de cada uno de los ayuntamientos nuestra propuesta es clara uno informe del gobierno vasco

y dos liberar el proceso de reconocimiento de la garantía del derecho a la vivienda

de esta ley un liderazgo claro por parte del gobierno

a desarrollar nuestra ley de vivienda eskerrik asko eskerrik asko martínez zaton

gracias señora presidenta señor martínez me pide más concreción y más definición le puedo decir cuáles son nuestras cuáles son las previsiones de plazo tampoco voy a descubrir nada nuevo además de lo que expuesto en

después de conocer la sentencia del tribunal constitucional hemos iniciado una ronda con todos los grupos

del departamento intercambiar puntos de vista intentar acertar

la línea a seguir de forma que desarrollemos ese decreto del capítulo noveno de la ley los contactos están iniciados se iniciaron

precisamente la próxima semana pues estará con ustedes con elkarrekin podemos también nos vamos a reunir próximamente con eudel porque

del futuro decreto y en ese sentido

porque la primera administración que tiene que actuar en la política

sobre la vivienda deshabitada son los municipios en la declaración de vivienda deshabitada en el alquiler forzoso y en su caso en la expropiación

en el canon solamente los ayuntamientos aunque la ley establece que el canon una vez que declare la vivienda deshabitada se debe de poner en marcha no es

es algo que se recoge en la ley pero en ese sentido la coordinación del gobierno

en eso tenemos que trabajar y además aprovechar todo el tiempo de tramitación del decreto todos los meses hasta la aprobación definitiva para tener bien encauzada la relación con los ayuntamientos garantizar que una vez que se apruebe definitivamente el decreto

porque hay ese engrase previo en la relación con los municipios estamos hablando de cuestiones muy sensibles desde la perspectiva social

y para eso lo mejor es integrar son sensibilidades posibles

y que permita que se pueda

presente año y como le decía queremos que la efectividad real del decreto

queremos en ese sentido trabajar durante este tiempo

difícilmente podrá finalizar todo el proceso de tramitación hasta el segundo semestre del año dos mil diecinueve porque aquí los plazos de tramitación son impepinables y duran lo que duran los informes duran lo que duran y cuestan lo que cuestan

trabajar en una relación muy directa con los ayuntamientos vamos a

de apoyo a los ayuntamientos que menos medios tienen para poder

tenemos ya una experiencia con eudel en ese sentido en lo que

y vamos a trabajar para poder formar e informar

y buscar las mejores formas de acuerdo con los municipios para poder

cuando desde este parlamento se encomienda a los ayuntamientos tareas y deberes es bueno no dejarles solos ni cargarles en la mochila la responsabilidad y el peso lo importante es hacerlo coordinadamente buscar

la complicidad la complicidad en el desarrollo de la ley que es una complicidad necesaria pero también la complicidad lo que supone

de recursos de apoyos necesarios porque eso es lo que nos va a permitir

de que la ley en lo que es la gestión de la vivienda deshabitada tenga una garantía de éxito en el futuro no hay que también trabajar

cariño a las instituciones locales que son la primera administración

eten dio cuatro mujeres bisabuela abuela

junio de dos mil dieciséis esta familia de mujeres se da cuenta al no cobrar que tienen la suspensión de la rgi sin previo aviso imagínense que van a por el salario y de repente

esta es la primera arbitrariedad en esta historia y el primer acto de maltrato institucional pero por ser tan frecuente

no deja de ser un claro abuso de poder sigamos septiembre de dos mil dieciséis reciben un requerimiento de documentación ocho documentos para cuatro personas total treinta y dos documentos una de estas mujeres acude a lanbide identificada con su pasaporte porque había perdido el dni todas sabemos que el pasaporte es un documento igual de valido

que no le vale y no le recoge la documentación porque le dicen que tiene que presentar la denuncia de pérdida o el dni para poder hacerlo sin embargo sí que había podido pedir el resto de documentación que iba a entregar

no le vale y no se los recoge no se los recoge en esta ocasión por no presentar el pasaporte se vuelve para casa y por tercera vez regresa a lanbide con la denuncia el pasaporte y una copia del dni

no le recoge la documentación un organismo de la administración pública niega a una ciudadana su derecho y obligación de entregar documentación siguiente abuso y situación insisto de violencia institucional la señora imaginamos que desesperada en este cuento que podría ser gracioso sino fuera por el drama que esconde acude a su trabajadora social que

en esta cuarta ocasión y por fin y solo con apoyo de un tercero pudo entregar la documentación entre una cosa y otra cinco

en ese momento lanbide les comunica en una carta que van a continuar suspendidas por no presentar en el plazo estipulado la documentación que le habían requerido

acudió en cuatro ocasiones a presentar la documentación de nuevo imaginamos que desesperada

en marzo de dos mil diecisiete cuatro meses desde la interposición del recurso y nueve meses sin cobrar se les responde que no que continúan con la suspensión en abril de dos mil diecisiete suponemos que asesoradas de nuevo ponen una queja en el ararteko en diciembre de dos mil diecisiete ojo

de que no pueden volver a retomarla y además no van a poder solicitarla en el plazo de un año en septiembre de dos mil dieciocho hace unos días dos años y dos meses después del inicio de este calvario

que la mujer no incumplió la ley resuelve que además la interpretación es extensiva y lesiva a los derechos de la demandante y además que supone una quiebra del principio de proporcionalidad artolazabal anderea

que esto vuelva a suceder y cómo va a reparar si es que este despropósito fuera reparable estos dos años y al menos tres meses sin cobrar que llevan estas cuatro mujeres

con estas políticas sociales patriarcales están ustedes poniendo en riesgo a las mujeres en situación de vulnerabilidad social y usted es la última responsable

ahora por favor trate de justificar su papel y el de lanbide en todo esto eskerrik asko guanche

lanbide tiene en cuenta señora guanche todas las recomendaciones del ararteko para corregir aquellas disfunciones detectadas siempre que estas se encuentren dentro de los límites de la normativa actual de las cincuenta y dos recomendaciones que recibimos en el año dos mil diecisiete veintisiete fueron aceptadas cincuenta y dos por ciento catorce discrepancias de legalidad

existen diferentes criterios en lo que es la interpretación que hace el ararteko de la que hacemos nosotros y once requieren de modificación

lo hace en el caso que usted ha traído hoy aquí y también lo hace en otros muchos casos que usted suele traer a esta cámara el de hoy

y a nosotros nos corresponde articular medidas y normativas

lógicamente la tenemos en cuenta y si la recomendación supera los límites

posibles futuras modificaciones de la normativa eskerrik asko

no las toma en consideración cómo va a reparar a esta persona

una vez de que ha habido un trabajo que hay un trabajo que usted

los servicios jurídicos con el objetivo de ir mejorando nosotros no tenemos especial ahínco en

cumplir con la normativa y cuando esa normativa no es adecuada o se puede mejorar lo que sí que hacemos es

nos presentan incorporarlas todas aquellas que puedan ser incorporadas con la ley actual en lo que es la recomendación del ararteko que hoy nos encontramos con las distintas versiones cuando menos interpretaciones de la situación de la unidad de convivencia

en los datos que en el expediente de lanbide constan únicamente tenemos constancia de que los miembros de la unidad de convivencia en este caso en este expediente son una madre y una hija mayor de edad

y de los datos que en el expediente nosotros tenemos en la recomendación del ararteko se determina que el hecho es no presentar el dni el que motiva la suspensión y en el expediente

se explica con claridad que se requirió a la recurrente que presentara la siguiente documentación de la madre

o de lo que han solicitado a la espera de su llegada certificado de pensiones contributivas

ante este requerimiento la recurrente acudió a la cita con lanbide

es decir la persona sí que tiene una serie de derechos pero no tiene parece ser ninguna obligación no

en este momento diciendo pero el hecho de no aportar ninguna información solicitada no exime del incumplimiento de la normativa vigente

por tanto dicha recomendación no se ajusta al límite de la normativa actual lo que sí hemos hecho

de una nueva normativa en la que se recoge una modificación del régimen sancionar y es en lo que estamos señora guanche

gracias presidenta buenos días consejeras consejeros señorías bien

interpelación que demuestra lo oportuno de las interpelaciones en algunos casos oportuno porque parece que el alcalde de vitoria acaba de responder

la consejera en una segunda comparecencia podrá explicarnos lo que exigía esta interpelación vamos a hacer un recordatorio hace

en este mismo sentido sobre la integración del conservatorio de danza

de vitoria en la red de enseñanza pública vasca y nos interesamos efectivamente sobre el asunto era una interpelación informativa en relación con el proceso no presentamos moción en la confianza de que se iban a dar los pasos definitivos para este

había pasado casi un año y hemos presentado esta interpelación que ya no quería ser tanto informativa como de exigencia

reiteración y de qué estábamos hablando de lo que ya este parlamento aprobó en dos mil catorce en relación con que se instaba al gobierno vasco a reconocer el patrimonio de la trayectoria profesional de ya

para consolidar un proyecto único y garantizar su futuro e instar en aquel momento dos mil catorce al departamento de educación política lingüística y cultura a acordar con el ayuntamiento de vitoria gasteiz que es donde se residencia la titularidad del conservatorio municipal de danza en el plazo de un año ya han pasado cuatro

asumiendo así su titularidad y adoptando para ello las medidas que sean necesarias

vuelvo a decir es una buena idea presentar interpelaciones como esta

hemos tenido también nuestro grupo presentó en estos presupuestos una partida en relación con los pasos necesarios para esa integración

parece que algunas cosas la oposición a veces también hace bien

que ahora mismo hace unos minutos acaba de responder a una parte de lo que se refiere esta iniciativa en relación con la integración al conservatorio de danza municipal josé uruñuela de vitoria y a su integración en la red pública de enseñanza luego le llamaré al señor alcalde para darle las gracias también por esa contestación

recordará la señora consejera pero ahora le toca a usted aquí darnos la explicación del proceso que se va a realizar

conocidos algunos de los detalles en los próximos meses en relación con esa integración

sus esfuerzos o los esfuerzos que usted nos anuncie pueden ser impulsados o pueden ser complementados con una moción que pueda salir del debate de esta interpelación

en esos cinco objetivos en relación con esa integración y también tenemos que decir que se conservatorio el conservatorio de danza en relación con los niveles

es único en euskadi por lo que tiene un valor verdaderamente singular esa es nuestra interpelación quiero recordarle que los objetivos a los que usted se refería eran objetivos que tienen que ver

de la disciplina el fortalecimiento de la danza el primero de ellos contemporánea dentro de la especialidad de la danza clásica y en coherencia y complementariedad con la oferta formativa

el segundo objetivo la ceración de signaturas optativas lo que ampliaría las posibilidades de opción y enriquecería

la formación el objetivo también el tercero de la coherencia interna en relación con los ciclos de dos cursos con la distribución horaria adecuada también hablaba

carga horaria del alumnado efectivamente algo importante de abordar y también se refería al planteamiento lingüístico en relación con la situación actual

nos llevaba a esta interpelación a cual es el propósito del departamento de educación para abordar en este curso dos mil dieciocho dos mil diecinueve el proceso de integración para que definitivamente el conservatorio de danza josé uruñuela se integrase en la red pública de enseñanza vuelvo a decir que algo han acordado algo que en el ayuntamiento no sabían nada hace poco que preguntamos pero ahora parece que algo

que nos explicará seguro en breves segundos muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

legebiltzarkideok egun on señor barrio las enseñanzas artísticas son para esta administración un elemento fundamental dentro de nuestras políticas educativas

en este sentido creo que es importante recordar que por ejemplo musikene cuenta con una nueva y moderna sede gracias al impulso dado también en anteriores legislaturas y que hace cuatro años pusimos en marcha dantzerti la escuela superior de arte dramático y danza de euskadi

y precisamente con la intención de seguir mejorando actualizando las enseñanzas artísticas desde el año pasado desde el departamento de educación hemos impulsado una reflexión en relación a ese futuro educativo como saben las enseñanzas artísticas engloban diferentes modalidades y contenidos

pero también de fotografía de diseño y de música y en concreto en lo que se refiere al territorio histórico de araba esa reflexión el trabajo realizado y la coordinación entre instituciones ya está dando sus frutos de hecho a continuación en otra pregunta que se va a formular voy a hacer referencia al acuerdo alcanzado hace unos días para dotar de contenidos artísticos y también vinculados a la formación profesional al antiguo convento de betoño

con otras instituciones en este caso con la fundación vital ya saben que en ese nuevo emplazamiento se va a situar

la escuela superior de diseño de euskadi por tanto otro ejemplo más de ese trabajo de reflexión y de actuación que comentaba y esa es la línea que hemos tomado y que vamos a seguir también en relación al conservatorio municipal de danza josé uruñuela como saben

ya sé que le hubiera gustado que ese cambio ya se hubiera producido pero sabe que este tipo de acuerdos requieren de una reflexión y posterior ejecución que no suele estar exenta de cuestiones a resolver la intención del departamento de educación y del ayuntamiento es el de firmar un convenio que posibilite la incorporación de estas enseñanzas de danza a la enseñanza educativa ordinaria estamos avanzando y nuestra intención es firmar dicho convenio

pero de momento me resulta complicado concretar más un acuerdo como este tiene varios componentes diferenciados y todos ellos se tienen que resolver hablamos de cuestiones relativas al personal evidentemente también a los contenidos curriculares a los cambios que posiblemente será necesario acometer en el plan de estudios y también a los espacios de los que se va a disponer

enseñanzas y que deberán cumplir los requisitos técnicos que se recogen en las normativas del gobierno vasco cada uno de esos puntos requiere su trabajo y análisis y en ello estamos desde hace ya un tiempo

aunque sé que anteriormente ya hemos tratado este tema me parece importante nuevamente volver a comentar que las enseñanzas artísticas de danzas regladas se imparten en el nivel elemental y profesional únicamente en el conservatorio municipal de danza josé uruñuela de vitoria gasteiz

el centro josé uruñuela imparte los cuatro cursos de las enseñanzas elementales de danza y los seis cursos de las enseñanzas profesionales normalmente el alumnado cursa los cuatro cursos de enseñanza elemental cuando está cursando tercero cuarto y quinto y quinto y sexto de educación primaria

de manera que al finalizar las enseñanzas profesionales pueden acceder a las enseñanzas superiores

se ofrecen además de la especialidad de interpretación de arte dramático la coreografía

siendo esto así en la reflexión llevada a cabo por el departamento en la que se busca una coherencia de la oferta de enseñanzas artísticas y una mayor visibilidad acorde a la apuesta que hace el departamento

para poder realizar una oferta completa y asegurar al alumnado vasco una trayectoria educativa

incorporar las enseñanzas elementales y profesionales que solo se imparten en el conservatorio municipal de danza josé uruñuela de vitoria gasteiz con una visión integradora y de acuerdo a la norma de referencia

el primer análisis del departamento se centró en analizar diseñar y proponer la revisión del plan de estudios del centro desde el punto de vista organizativo el plan de estudios actual debe evolucionar hacia una orientación que permita un perfil de salida del alumnado más acorde

la principal característica del plan de estudios de este centro es la configuración de unas enseñanzas integradoras y polivalentes donde dentro de una sola especialidad lo clásico y lo contemporáneo tienen prácticamente el mismo peso cualitativo y cuantitativo

con lo que se asegura un itinerario formativo coherente entre las enseñanzas profesionales y las enseñanzas artísticas superiores de danza

considerada como la mejor formación básica necesaria para la preparación de futuros profesionales de la danza

debe avanzar hacia una progresiva ampliación de la oferta en euskera debiendo dar respuesta a la demanda de euskaldunización como consecuencia del progresivo incremento del alumnado que cursa sus estudios

en su principal área de influencia geográfica y con el planteamiento lingüístico de los estudios superiores

por tanto en respuesta a su pregunta es propósito del departamento de educación seguir dando pasos para la integración efectiva del conservatorio de danza josé uruñuela en la red pública vasca de enseñanza

una vez acordada entre las partes y autorizada por sus respectivos órganos de gobierno

como ve este también es un resultado de la colaboración interinstitucional eskerrik asko uriarte andrea

gracias presidenta gracias consejera es un avance

institucional y también fruto de la perseverancia de la oposición y de los grupos que desde hace mucho tiempo pensábamos en esta necesidad de la integración de exigirlo

compromiso que se tenía que haber llevado a cabo antes

que en este momento a través de esa exigencia se ha podido ver que se va a materializar

hay algunas preguntas que habría que

en relación con cómo se va a desarrollar porque ya hemos visto que efectivamente de la comparecencia del señor urtaran y de la suya propia en esta primera intervención pues quedan flecos

hipótesis de trabajo un planteamiento previo una introducción al trabajo de la misma manera

ese proceso de integración en la red pública y ahora queda es la asunción de ese compromiso pero sin concretar porque usted ha dicho que

no puede ser complicado concretar más si ustedes las dos instituciones llamadas

abordar este proceso que nosotros les hemos exigido pues es necesario abordar la concreción por lo menos

tres preguntas en relación con la concreción de este proceso va a ser la firma del convenio antes de fin de año es importante saber

estos temas con el ayuntamiento de vitoria con el departamento correspondiente o con el señor alcalde sabrán

este convenio segundo cuándo va a ser la fecha de la integración después de la firma de ese convenio también tendrán que tener una fecha aproximada

definitivamente de la titularidad municipal a la titularidad del gobierno vasco y eso también tiene que estar previsto y esa es la concreción que nosotros también queremos puntualizar

iniciativa y por último cuándo después de la fecha del convenio después de saber la fecha de la integración va a haber inclusión en los presupuestos de dos mil diecinueve de partidas destinadas

a la integración del conservatorio de danza josé uruñuela de vitoria gasteiz

en estos presupuestos es decir tres preguntas muy claras a lo que usted ha dicho que es bueno ya están trabajando sobre esa posibilidad sobre ese compromiso y sobre ese proceso es decir tres preguntas para que usted nos diga efectivamente

que eso es así y que antes de diciembre o antes del treinta y uno de diciembre se va a firmar el convenio

va a haber la integración y por supuesto en ese sentido en los presupuestos

no sé lo que me contestará pero en cualquier caso yo sí que le voy a ayudar a usted presentando una moción que aprobaremos seguro entre todos para que el año que viene la integración sea efectiva muchas gracias

tal y como le he trasladado en mi primera intervención el proceso de integración no es un proceso sencillo y se dispone de un borrador de convenio en el que estamos trabajando a compartir

y como ya le he dicho en mi primera intervención nuestra intención es que antes del último trimestre de este año se proceda a su firma

bermeekin le puedo asegurar señor barrio que su deseo y el nuestro son el mismo

dantzerti y que por ello desde un punto de vista de arquitectura educativa

con las posibilidades de coordinación y de impulso mutuo que estos centros se pueden dar entre sí

es un valor en sí mismo que desde el departamento de educación queremos aprovechar le repito que no es fácil determinar el tiempo que vamos a necesitar para llevar a cabo el cambio pero mi intención es que el departamento de educación pueda asumir la gestión de josé uruñuela

le repito que ese tránsito requiere de un trabajo importante pero también es cierto que los últimos meses hemos avanzado en cuestiones técnicas
espero que ese cambio se pueda llevar a cabo a lo largo del próximo curso dos mil diecinueve dos mil veinte eskerrik asko uriarte

gracias presidenta hola de nuevo señora consejera señoras consejeras

bien ante la colocación de una pancarta en homenaje a la banda terrorista eta la semana del veinticuatro de septiembre si

mal no me fallan las fechas en la facultad de comunicación de la upv

en la que se utilizaba terminología estética de la banda yo no tengo la habilidad de otros parlamentarios en sacar fotos y poner así pero bueno

imágenes en los medios de comunicación vuelvo a decir terminología y estética de la banda y ante la no retirada inmediata de la misma pancarta

por parte de las autoridades universitarias pues sí que me gustaría que la señora consejera de educación del gobierno vasco nos dieses respuesta a la siguiente pregunta parece que estamos en malos días para los valores de la convivencia y de la educación

es la razón por la que la pancarta de recuerdo y homenaje a eta no fue retirada

las autoridades de la upv ehu del campus de leioa han trasladado al departamento de educación del gobierno vasco que disponen de un protocolo de actuación en el que se determina

mensajes o pintadas que se realicen en las instalaciones de la universidad de acuerdo a dicho protocolo si los mensajes de esos soportes

o si en los mismos aparecen logotipos de entidades ilegales

en el resto de los casos los soportes se retiran de forma periódica concretamente los viernes por la tarde la upv ehu en aplicación de este protocolo

una vez analizados el mensaje y los símbolos de la pancarta encuadró la misma en la segunda categoría tomando la decisión de proceder a la retirada de dicha pancarta

que no fue necesario ya que la misma fue retirada ese mismo día veintisiete no estando desplegada

estuvo más tiempo del que usted nos ha dicho y fue un acto de enaltecimiento de eta le ruego que se lo traslade de nuestra parte a la rectora o al decano

o a la persona que sea responsable que es lamentable la actitud de la universidad del país vasco en este sentido

dadas en relación con la no retirada inmediata es lamentable ese segundo protocolo es decir no forma parte del primer protocolo porque no se entiende

donde se pueden analizar expresiones no

a la comunidad universitaria y a la sociedad ese es el elemento fundamental mire efectivamente le pedimos que traslade ese desasosiego

por parte de la universidad del país vasco y por parte de sus directores

se minusvalore estas actitudes hostiles que representan las pancartas

que en el ámbito universitario se han hecho en relación con determinados presos o de determinadas terroristas homenajes

y le exigimos que además de esta información que ha recabado exista una investigación a fondo es decir esa explicación lamentable

primero están las cosas importantes y luego hay un segundo protocolo para desarrollar otras cosas menos importantes en relación

a la comunidad universitaria es algo que debe usted exigir inmediatamente exigimos además saber quien ha colocado esa pancarta porque también la investigación que tiene que hacer la universidad y que entendemos que usted se lo puede encargar tiene que saber no sé si a través del departamento de seguridad o de quien tenga que ser tiene que
decirnos quien colocó ahí esa pancarta muchas gracias eskerrik asko barrio jauna uriarte anderea zurea da hitza

la última recientemente el pasado mes de junio en respuesta a una pregunta por usted formulada el posicionamiento de nuestro gobierno es claro y de condena y rechazo de cualquier acto de legitimización o enaltecimiento del terrorismo ni cualquier acto que no respete el suelo ético y puede

en todo caso el acto al que usted se ha referido y siempre de acuerdo a lo transmitido por la propia universidad se trataba de una reunión de un grupo de personas desconociéndose el motivo de la misma

dentro del horario lectivo por lo que no hay que realizar reserva del mismo el acceso no está restringido y el servicio de seguridad solo actúa en caso de riesgo para la integridad de las personas o bienes es objeto de su protección esta es la información que nos ha sido traslada por el cuerpo directivo de la universidad

hace dos semanas finalmente se planteó un uso público del edificio

supongo que la señora consejera es conocedora de los intentos primero del alcalde maroto y después

tenemos la sentencia del veintiséis de julio de dos mil dieciocho que era la tercera vez que un juzgado daba la razón a euskal herria bildu en la defensa de lo común y de lo público

que en la modificación de la permuta de maroto de dos mil catorce y la de urtaran en dos mil dieciséis

la finalidad de la modificación de la permuta esa que hemos conseguido anular

la fundación bancaria al autorizarle la enajenación parcial y o total del inmueble

una vez recuperado el control público del edificio y la obligatoriedad por tanto de respetar las condiciones de la permuta original queremos ser colaboradoras además de garantes

por eso queremos conocer las intenciones de gestión del mismo kudeaketa ereduan publikoaren defentsa instituzioen arteko elkarlana eta abar ea planteatzen duzuen

con sentencias que así lo confirmaban con alcaldes también de partidos diferentes el pp y el pnv

y precisamente porque se daba una perversión en la interpretación de lo que puede ser una cooperación público privada

lo público a lo privado y eso es lo que nos preocupa y sobre eso le preguntábamos nos preocupa en qué términos se ha acordado el alquiler o mantenimiento de los edificios sabe que la adquisición del edificio fue del ayuntamiento y los términos de la cesión también son muy claros no es para que una entidad bancaria se lucre sino que precisamente era para desarrollar determinadas tareas por el interés común pero es que como nos inquieta mucho estos antecedentes creemos que es muy importante aclararlo

alteración sustancial del espíritu inicial del contrato y desde luego mi grupo

por eso lo que queremos es saber las condiciones de la gestión del mismo

cómo qué modelo de gestión va a ser usted ha dado parecidos datos en el sentido de la pregunta anterior respecto

tenían muy avanzado y en el mismo sentido le hacemos la pregunta del modelo de gestión queremos saber cómo es el acuerdo

incluidos en la sentencia que iba en contra de los cambios de la permuta la legislación avala además que no se puede producir la pérdida de control del patrimonio municipal

queremos saber cuál es el modelo de gestión que plantea su departamento para desarrollar los proyectos que nos parecen

en todos los sectores y ámbitos a necesidades contemporáneas y retos inminentes el diseño constituye un factor clave para la mejora de la competitividad económica de un país

con vistas a fomentar la competencia de sus producciones en mercados tanto nacionales como internacionales en sus nuevas instalaciones tknika ampliará los proyectos que ha desarrollado hasta el momento dando respuesta a nuevos sectores del campo de las industrias creativas y su labor se coordinará

los nuevos espacios estarán destinados a la creación a la cocreación al encuentro a la experimentación al desarrollo de proyectos

compañeros y compañeras parlamentarias es una pregunta

en este complejo asunto de las ope fraudulentas no parece que se ha tocado nada en los hospitales

y eso es la pregunta quería coger este aspecto que en las varias comparecencias que usted ha hecho señor consejero y de las polémicas algunas complejas y difíciles en las que usted ha participado junto a nuestros grupos políticos

por qué no cesa a ningún jefe de servicio que hay sospechas evidentes que han participado en el fraude de los exámenes

breve no tanto en lo referente a la actual ope

diligencia y prudencia investigando y actuando de forma proporcional a los hechos comprobados respetando el principio de inocencia y cumpliendo todos los compromisos adquiridos con esta cámara

ocho expedientes informativos y siete expedientes disciplinarios que no han concluido se ha informado puntualmente a la comisión de seguimiento a los grupos parlamentarios

de forma continua y máxima

seguro que sabe por qué no hemos hecho todavía lo que no ha pedido porque no se puede eskerrik asko darpón jauna uria jauna

señor consejero gracias por la contestación conocíamos ya lo que ha contestado el problema es que

es que unos cuantos jefes de servicio filtraron los exámenes o hay sospechas fundadas de que lo hicieron

porque no le hicieron caso porque usted y maría jesús múgica dijeron tenemos una ope difícil tres mil trescientos veinticinco plazas

ustedes dijeron queremos que no pase nada ustedes dijeron y hubo unos cuantos jefes de servicio que no hicieron lo que iban a hacer porque usted dijo que no se hiciese eso pero hubo otros cuantos los listos de siempre

algunos jefes de servicio pasaron los exámenes a médicos que trabajaron con contrato de carácter interino en sus respectivos servicios

y usted lo sabe ningún jefe de servicio ha notado el aliento del consejero en su cuello ninguno

es que con opiniones no se toman decisiones no se gobierna con opiniones

yo no le estoy planteando sanciones a los jefes de servicios ni ingresar en prisión

todos vamos a esperar y todas estamos hablando

es la mejor de las diecisiete comunidades autónomas aquí no pasa nada no puede ser

lo básico es fortalecer el prestigio de osakidetza y lo básico es que la gente que no ha sido leal que son verdaderos padrinos en los hospitales

que son fraudulentos y que le han metido a usted en este lío pues que sepan que no tienen nada que hacer en osakidetza que se ha acabado debe cesarlos

que no se cree lo que está pasando es su oportunidad de rectificar tiene usted ya sabe el artículo o la ley

artículo treinta treinta y uno treinta y cuatro treinta y cinco disposiciones transitorias que hablan sobre jefes de servicio

que hablan sobre la necesidad de revisar su puesto de trabajo el consejo de

si tienen que cesar no sé cuántos jefes de servicio o si tiene usted que cambiar de discurso mire nosotros hemos asumido nuestra responsabilidad para aclarar lo sucedido para finalizar con garantía la ope y en paralelo para mejorar el modelo de selección y provisión de profesionales en osakidetza usted ha pedido aquí y le voy a hablar textualmente porque está también en la justificación de la pregunta el cese preventivo

de las preguntas de exámenes el cese preventivo

ante sus afirmaciones que ha condenado a los vocales de diecinueve tribunales jefes de servicio o adjuntos

por doce vocales cada tribunal seis suplentes y seis titulares y entiendo que habrá ido usted a la fiscalía con los nombres de los profesionales y las pruebas de los delitos cometidos porque si no son totalmente inaceptables y carentes de la mínima ética

nosotros actuamos con rigor objetividad y prudencia respetamos a los profesionales señor uria

respetamos la presunción de inocencia de vocales y de opositores y sobre todo

sean jefes o no nuestro principal activo lamento profundamente que usted

desde su experiencia se permita realizar este tipo de acusaciones sin fundamento créame yo no me atrevería por nuestra parte le garantizo que osakidetza va a continuar poniendo

que es nuestro objetivo prioritario en este momento respetando los derechos de todas las personas y trabajando en nuevas medidas para garantizar mejor la transparencia y la igualdad de oportunidades en futuras ope

es nuestro compromiso es nuestra obligación y es lo que vamos a hacer señor uria eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako

gracias señora presidenta señor consejero veintitrés mil folletos en inglés para promover

oficinas turísticas que han tenido que ser retirados parece ser que cinco mil ya habían sido repartidos en oficinas y

retirados porque sitúan a euskadi en cuenca un error en la contraportada del folleto en la que aparecen dos mapas uno arriba que corresponde a la comunidad autónoma vasca y otro abajo que pretende ubicarnos en europa

señor consejero qué valoración hace de esta situación y estos hechos eskerrik asko lópez de ocariz andrea erantzuteko

eskerrik asko mahaiburu andrea señora lópez de ocariz en efecto el folleto al que hace referencia es un folleto desplegable que incluye un mapa de carreteras de la comunidad autónoma

y que se hace en seis versiones idiomáticas diferentes en castellano en euskera en inglés en francés en alemán y en italiano en concreto la errata se produce en la contraportada de la versión en inglés en la tirada de marzo de este año se trata de una tirada con un diseño actualizado que incorpora el logo del producto de touring por euskadi

la primera publicación con ese diseño actualizado fue la versión en castellano que se hizo en noviembre pasado

el error de composición referido cuando conocimos la incidencia en primer lugar contactamos con el servicio central de publicaciones que ya había bloqueado el reparto de folletos y que efectivamente nos comunicó que del total de la tirada habían repartido por peticiones cinco mil trescientos y en los almacenes permanecían diecisiete mil setecientos ejemplares en segundo lugar contactamos con los puntos de reparto básicamente oficinas de turismo

una comprobación del proceso interno seguido para el rediseño del folleto por si el error se encontraba ahí es un proceso además documentado vía email entre un técnico de basquetour y una empresa vitoriana de diseño gráfico pues bien analizado ese proceso en noviembre de dos mil diecisiete se da el aprobado final a la propuesta de la empresa que

que estaba correcto en todas sus versiones idiomáticas a partir de ahí la empresa envía lo que se conoce como artes finales para su

es claro que en la tarea de impresión hubo un problema de composición no se refiere tanto al puntero cuando que el mapa si se comparan las distintas versiones se ve

un zoom y eso es lo que descoloca el puntero cualquiera que conozca la

entiende de donde proviene el error en cualquier caso es un error ya ajeno a nuestra intervención entiendo también que las labores de impresión estas cosas ocurren a veces los duendes de la imprenta

en el vocabulario del gremio pero claro mi valoración no puede ser positiva de la errata en sí

que considerando el volumen de trabajo de impresión que generamos en la actividad de promoción turística desde el departamento estamos razonablemente satisfechos con el balance general de estos años

de ejemplares de distintos folletos de promoción turística cuya reducción es para nosotros el objetivo importante en la gestión del departamento apostando como sabe

y de hecho puedo decirle que en los dos años de esta legislatura la producción se ha reducido
sensiblemente a quinientos cincuenta y nueve mil folletos eskerrik asko

efectivamente al departamento de gobernanza pública y autogobierno le podemos reprochar lo que algunos lectores escribían en los comentarios de los diarios digitales así promueve el gobierno vasco a las empresas vascas imprimiendo con empresas de granada que ni cotizan aquí ni generan empleo aquí se les llena la boca

aquí y luego contratando y comprando fuera pero señor consejero usted reconoció el error pero insistió que la culpa no es de la consejería de turismo usted apunta que es el servicio de publicaciones quien se encarga de la impresión y que es bajo la responsabilidad del departamento de gobernanza pública y autogobierno donde se produce el error señor consejero desde el grupo popular

no lo cometen ustedes pero la responsabilidad de supervisar el material que se va a distribuir que proyecta la imagen de euskadi en el mundo es exclusivamente suya es su responsabilidad ustedes tienen la partida para este concepto

de que se ejecute y no valen balones fuera desde el grupo popular calificamos de infantil el comunicado que se departamento hizo público

culpabilizando al servicio publicaciones señor consejero el yo no he sido ha sido fulanito es de patio de colegio parece que están ustedes

menesteres que no son los propios de la gestión de una consejería su gabinete parece más bien una plataforma de lanzamiento para saltar a la arena municipal casi todos quieren ser alcaldes estaría bien que tomasen lo antes posible una decisión y

de liderar la consejería y de formar parte de su gabinete lo haga al cien

señora lópez de ocariz el error no está en publicaciones le he dicho que el problema está en la composición y le he hablado de los duendes de la imprenta eso

se nos ha ofrecido para solucionar el problema un procedimiento a partir de un sistema de pegatinas sin cargo para el departamento y minorando además los costes medioambientales que supondría la retirada completa de la tirada y su reimpresión y nosotros con eso nos damos por satisfechos si usted quiere

otras cuestiones es su cuenta yo doy cuenta de la gestión
mientras sea consejero del departamento que dirijo y nos encargamos y eso es lo que comprobamos de que efectivamente los folletos estuvieran bien eskerrik asko

nada menos por tanto que ocho meses antes de que esta consejera asumiera por primera vez la responsabilidad de dirigir el departamento de seguridad con un proceso

con una investigación que correspondía exclusivamente a la autoridad judicial como sabe perfectamente ya lo hemos comentado en otras ocasiones lo he explicado yo

no permite que estando un procedimiento judicial en marcha se realice una investigación interna ahora estando estas semanas en pleno desarrollo del

con testigos e imputados declarando en el juzgado no procede tampoco hacer valoraciones ni de la instrucción judicial no procede sobre todo por respeto a la propia autonomía judicial e independencia judicial y por todo ello yo creo que debemos evitar desde este estrado desde este parlamento

interferir en el proceso judicial en este juicio oral cuyo objetivo es determinar qué ocurrió

y saber quién fue el autor material del disparo que causo

y saber en qué circunstancias se produjeron esos hechos eskerrik asko eskerrik asko

y le voy a decir además en la primera conversación que tuve con usted en este parlamento en la comisión de seguridad cuando le pregunté precisamente por el caso cabacas qué me dijo

de dos mil trece yo acabo de llegar a este departamento y acabo de llegar a esta responsabilidad yo

u otras personas respecto a cualquier actuación yo respondo políticamente de mis actuaciones yo no voy a asumir

y ha pasado el tiempo y resulta que aquellos otros ahora son sus compañeros de gobierno y ha pasado el tiempo y si algo se está comprobando es que precisamente no ha asumió entonces y no asume ahora ni responsabilidades políticas ni de ningún otro tipo yo no le pido interferir en la justicia le pido saber qué ha hecho antes de que el juicio público

cabacas y quiero saber si la actitud que ha mantenido en ese tiempo ha sido

buscaron ampliar las acusaciones o evitarlas buscaron ofrecer datos que ustedes podían tener

buscaron esclarecer los términos oscuros o taparlos más y embarrarlos

pero sin embargo en la sala todavía están sus abogados y quisiera saber qué hacen ahí si están asistiendo y aconsejando a los acusados o a los testigos de la ertzaintza o están velando por los intereses de verdad y justicia de la familia cabacas

o por el encubrimiento y es sobre esto sobre lo que le pido una valoración y usted me dice que no voy a asumir las responsabilidades políticas

me repite yo dejé en este estrado veintidós preguntas que

algunas tal vez se respondan ahora en el juicio que se está celebrando pero a otras todavía habrá que darles respuesta izan ere

le aseguro que desde el ámbito de responsabilidad que yo represento hemos aportado todo lo que ha sido solicitado por la jueza conforme avanzaba la instrucción

hemos contribuido con todo lo que se nos ha solicitado le recuerdo que el departamento puso a disposición desde el primer momento tanto de la jueza como de la fiscalía cinco a su disposición como policía judicial para ayudar en la investigación hemos aportado grabaciones informaciones imágenes del lugar documentos informes

aspectos formativos hemos contribuido con todo con todo insisto lo que la jueza ha considerado necesario y con todo lo que la audiencia provincial ha estimado procedente solicitar para completar precisamente lo que constituye hoy la base de este juicio oral y en esto no me atribuyo ningún mérito ningún mérito propio señor el departamento ha cumplido con lo que tenía obligación siguiendo paso a paso y escrupulosamente

hemos cumplido con la obligación de contribuir a esclarecer lo que ocurrió aquella noche con el fin de facilitar que se sepa la verdad

callejón como he dicho anteriormente las circunstancias que produjeron los hechos que causaron la muerte de iñigo cabacas liceranzu por tanto la

hemos hecho todo lo que se nos ha solicitado desde quien dirigía la instrucción y en el momento lo ha solicitado por tanto hemos hecho todo lo que la investigación ha solicitado para esclarecer el hecho el caso

señora san josé en el mes de junio se le preguntó en esta misma cámara por el servicio de justicia restaurativa

investigando esa adjudicación porque ese expediente a juicio de los grupos de la oposición

usted nos dijo que podíamos estar tranquilos y respecto de los trabajadores usted nos dijo que había abierto una línea de negociación con la nueva adjudicataria para que continuaran en sus puestos de trabajo a mí eso me dejo perplejo yo no entiendo cómo si hay un concurso que es público si hay una empresa que es la adjudicataria unas condiciones que están en el contrato qué ofrece usted en esa negociación

qué le ofreció a la empresa para que continuaran trabajando estos profesionales

han loado su labor han hablado de su gran profesionalidad les ha puesto con ejemplo y como modelo se les ha premiado en muchos sitios

a finales de agosto se produce el cambio de la empresa y más de la mitad de la plantilla se va a la calle y los que se quedan encima no son los mediadores son el personal

visto el éxito de su negociación qué solución les propone a estos

realizada para establecer sustituir el servicio de justicia restaurativa se ha efectuado de manera

cualificados efectivamente el pasado veintiocho de agosto se implantó el servicio en las tres capitales vascas el día anterior se había firmado el contrato de servicio correspondiente entre el departamento de trabajo y justicia y la entidad

convocado para la creación de este nuevo servicio tengo que aclarar que el contrato pudo firmarse después de que el órgano administrativo de recursos contractuales de la comunidad autónoma de euskadi en resolución dictada el veinte de agosto

el recurso interpuesto por la entidad adosten contra la adjudicación del contrato y levantara la suspensión automática del procedimiento como he repetido

este servicio venía a sustituir al de mediación intrajudicial que se prestaba por el gobierno vasco desde el año dos mil siete y he expuesto en esta tribuna también las razones de esa decisión

de un servicio a otro se hizo sin mayores incidencias salvo las derivadas de la transmisión de expedientes por parte del anterior servicio de mediación intrajudicial únicamente en el caso del servicio que se presta en el palacio de justicia de vitoria se produjeron hechos de otra naturaleza

recibidos con evidentes signos de tirantez por parte de alguno de los trabajadores de la antigua adjudicataria estas personas se niegan a abandonar los puestos por lo que a fin de evitar una situación más tensa

el día veintinueve de agosto la responsable del irse euskadi va nuevamente a las dependencias habilitadas para el servicio sin que se produjera incidente alguno

se pone en marcha en los tres territorios siguiendo el plan de trabajo formulado que incluye la coordinación de los equipos la atención en los partidos judiciales

que será revisado y completado con el protocolo elaborado y pendiente de difusión entre todos los operadores jurídicos eskerrik asko

decir que la transición se ha llevado a cabo de forma natural y ordenada y me pone el ejemplo de vitoria los trabajadores del servicio de mediación intrajudicial fueron desalojados por la ertzaintza

para usted señora consejera que cuando los trabajadores piden que alguien del departamento de justicia acuda al servicio para dar las explicaciones para ver cómo se quedan los expedientes cómo están los ordenadores cómo está todo el material desde el departamento que usted dirige se dice que no va a ir nadie

para desalojarles una transición normal natural

termina con los trabajadores en el juzgado de guardia en el palacio de justicia depositando las llaves y las tarjetas de trabajo porque nadie les recibe

y a los dos días reciban un burofax de un responsable de un funcionario de su departamento acusándoles de robo de material

si no deponen su actitud a eso a usted le parece natural normal

muy diferentes precisamente estos trabajadores del servicio del palacio de justicia de vitoria hacían el doble

cuatro veces más que los de gipuzkoa y ustedes dicen que no dan el perfil que no son buenos y se tienen que ir a la calle y no solamente nadie de su departamento la cara y se presenta allí

y les amenazan con ir a los tribunales me parece señora san josé que las explicaciones de este proceder normal y natural de su departamento las va a tener que dar a parte

que el nuevo servicio de justicia restaurativa está funcionando adecuadamente además

servicio y además tenemos que atender a los nuevos contenidos de ese servicio que incluye

y para atender a esos nuevos contenidos es necesario contar con un personal adecuado y con las competencias y

dar ese servicio y le aseguro que el personal que tenemos y el personal que se ha quedado del anterior servicio responde a esas necesidades con lo cual pienso que desde luego estamos cumpliendo

con las necesidades que requiere ese nuevo servicio de justicia restaurativa entonces ya le he explicado que no estamos en el anterior servicio de mediación intrajudicial estamos en nuevo servicio de justicia restaurativa con lo cual los contenidos de ese nuevo servicio
los requisitos no los cumple todo el personal que anteriormente trabajó eskerrik asko sailburu anderea amaitu da denbora